legebiltzarkideok orbegozo jauna egun on guztioi al inicio de la legislatura

a la que nos comprometimos a dar respuesta los usuarios y usuarias de nuestros centros de salud y ambulatorios se quejaban del mal funcionamiento

no estaban satisfechos con la atención automatizada que recibían cuando llamaban al centro de salud para pedir cita o médica enfermero o enfermera o cuando llamaban simplemente para hacer una consulta había problemas para completar una cita a través del sistema automatizado nuestro principal grupo de usuarios las personas mayores

la mayoría de las personas acababa desplazándose a los centros de salud

en las áreas de atención al cliente esta queja la tuvimos que escuchar una y otra vez no podíamos permitir que un gobierno que tiene un compromiso

en uno de sus servicios de referencia y mejor considerados por la ciudadanía no pudiera organizar la cita telefónica en condiciones estoy seguro de que sus señorías me entienden perfectamente porque muchos de ustedes habrán hecho uso del servicio automatizado

escuchado las quejas de ahí que una de nuestros primeras tareas

menos del quince por ciento de las llamadas podían culminar la cita con éxito y estamos ya dando una respuesta a esta queja argi geneukan

las personas vuelven a ser atendidas por personas así en araba desde el diecinueve de septiembre

está ya totalmente implantado a día de hoy el noventa y seis por ciento de las llamadas telefónicas finalizan con éxito sus citas para que se hagan una idea les diré que en araba estamos atendiendo una media de tres mil llamadas diarias y desde el pasado cuatro de noviembre

está ya implantándose en gipuzkoa y a partir del diez de diciembre iniciará su despliegue

de esta manera en las dos primeras semanas del año que viene

volverán a ser quienes atiendan personalmente a todos los usuarios y usuarias que soliciten cita en

por citar las principales ventajas les diré que con el nuevo sistema

de un modo más personalizado es más eficaz porque el éxito de conseguir cita cuando se llama es muchísimo más alto

de mantenimiento de líneas y además facilita la autonomía de gestión de la demanda en las comarcas de atención primaria la semana pasada

el responsable de la cita me dijo lo que no ha pasado nunca muchas personas dan las gracias a los administrativos

cuando llaman por teléfono porque consideran que es muy gratificante tampoco nuestra intención ha sido desechar el sistema automatizado hay aspectos en los que tiene ventajas no podíamos despreciar

efecto de la mal llamada crisis ha caído en este país serían muchas innumerables las empresas que podríamos citar

etcétera pero por sus orígenes por su compromiso y por su arraigo social a parte de por sus valores y trayectoria no es menos cierto que fagor representa el más grave toque de atención

ante esta situación que tiene causantes y responsables tanto internos y habrá que analizarlo como externos y paganos los trabajadores cooperativistas y eventuales de fagor y las empresas auxiliares desde euskal herria bildu hemos visto con suma preocupación diría yo la falta de liderazgo y visión estratégica de este gobierno

la estrategia por lo tanto ha sido conjunta y participada por la propia empresa

las entidades financieras y las instituciones públicas todas las actuaciones desarrolladas por el gobierno vasco se han ajustado de forma estricta al marco legal

un plan de viabilidad el gobierno ha actuado para tratar de garantizar la viabilidad de la empresa señor matute hace once meses

se comprometieron presentaron un plan de viabilidad cifrado en doscientos sesenta y tres millónes de euros solicitaron veinticinco al gobierno vasco y coparticipamos en la decisión hicimos lo que teníamos que hacer

hemos trabajado juntos nuestra propuesta es mantener la misma estrategia orientada ahora a minimizar el impacto social y mantener la actividad que resulte

la posición que entendíamos que tenía este gobierno usted ha trasladado aquí que nos reafirman en lo que hemos dicho usted ha hablado de minimizar y ha hablado de marco legal

a las exigencias del marco legal un marco legal que convendrán con nosotros en que es

absolutamente desequilibrado porque favorece los intereses empresariales en detrimento de los intereses del conjunto de la ciudadanía y fundamentalmente la clase trabajadora y esa es la realidad

y defraudados salimos de la misma es decir cuando uno opta por ser notario fedatario de una realidad donde el desequilibrio es tan evidente entre la parte empresarial

frente a los trabajadores y trabajadoras la posición no es una posición justa

activa o proactiva en la reparación de las desigualdades que genera esta mal llamada crisis esta crisis financiera provocada e inducida por quienes quieren ganar más a costa de la mayoría decíamos que nos sentimos defraudados porque nuevamente constatamos la total falta de dirección de liderazgo de rumbo y de estrategia de un gobierno

lo que dice es que sus limitaciones se las marca el rango legal el marco legal

se esconde la inacción del que deja hacer en una realidad desigual y mientras tanto el país

francia a través de su acción en brant y del fondo de inversión que ha creado está señalando

de fagor que se rescaten a través de la intervención pública del rescate público todas aquellas partes de las líneas que puedan ser productivas y que se cree una nueva cooperativa que mediante un plan integral y a través de la ayuda financiera desde lo público y también de las entidades que tenían que haber sido claramente públicas como kutxabank

aportando fondos y que recoja los cooperativistas hoy afectados y también sin desatender a los trabajadores no cooperativistas para que se pueda seguir manteniendo
ese tejido industrial en este pueblo y con carácter general la creación de un fondo estructural que garantice la viabilidad del sector estratégico eskerrik asko matute jauna erantzuteko

mire señor matute yo no sé cómo entiende usted el derecho europeo de la competencia

laguntzeko konpromisoari eutsiko diogu señor matute la empresa y la corporación han decidido cerrar

al concurso de acreedores todas las instituciones pública que hemos contribuido

lo deseable es que la estrategia siga siendo conjunta primando los objetivos que compartimos minimizar el impacto y el efecto sobre el empleo en esta empresa y en todo su entorno incluidos los proveedores y las empresas auxiliares
mantener la actividad que cuente con valor añadido y que pueda ser viable vamos a seguir comprometidos eskerrik asko lehendakari jauna

seis de noviembre en ganbara fue un reflejo de todo lo que nos queda por recorrer en euskadi para construir la convivencia hiritarrak

no se puede dejar este tipo de opiniones que se expongan sin más existe una línea editorial en e i te be acaba de ratificarla además su directora general en su plan estratégico donde se compromete a contribuir activamente a la sensibilización social por la deslegitimación del terrorismo

debe guiar política informativa atendiendo a la propia realidad informativa

de incontestable interés informativo que han sido tratados y analizados el periodo de dos años de paz tras el fin de la actividad de eta y la derogación de la doctrina

estos hechos se abordan partiendo de una premisa básica en los medios de comunicación de e i te be las informaciones nunca

e i te be mantiene un compromiso categórico con el reconocimiento y la atención de las víctimas y la convivencia pacifica argi erakutsi zuen beste behin ere

junto con presos de eta va a poner en la calle también otro tipo de asesinos y criminales de otro tipo de delitos igualmente injustificables y sinceramente

ni veríamos bien que se diera una entrevista a estas personas y que no existiera un contrapeso

de ese violador o de esos asesinos por lo tanto no queremos pensar tampoco que podríamos asistir por ejemplo a una entrevista a un torturador

de sus hechos delictivos no exista un contrapeso en esa misma entrevista que es lo que asistimos la otra noche en el programa de ganbara y desde luego no vamos a entrar aquí a valorar el valor informativo porque es una cuestión que efectivamente no se ha resuelto entre los profesionales de la comunicación pero desde luego en e i te be

asimismo lo ha declarado y en una de sus conclusiones dice claramente los profesionales de e i te be debemos cumplir nuestra misión de informadores sin caer en las estrategias de quienes violan los derechos humanos asesinando extorsionando o acallando a los que se oponen a la acción del terror y coincidimos con esta visión los socialistas como coincidimos con la directora del ente en teoría

es una tele institucional que tiene un papel fundamental en esta comunidad autónoma qué van a hacer ustedes para que esto no vuelva a ocurrir eskerrik asko mendia andrea

informativa a lo largo de los meses de septiembre octubre y noviembre no es un hecho aislado

elkarrizketatzen dira también se contactó con distintos jueces de la audiencia nacional y del tribunal constitucional

el cuatro de noviembre el programa ganbara entrevista a diferentes representantes de colectivos de víctimas en concreto a maite pagazartaundua josé vargas y rosa rodero

y mari mar blanco declinaron la invitación y el seis de noviembre se entrevistó en el mismo programa ganbara a miembros del colectivo etxerat

en la serie de misiones realizadas en torno a los dos hechos noticiosos ya mencionados

de estas entrevistas se planteó estrictamente desde el lado humano dispongo aquí del cuestionario de la entrevista hubo preguntas como cómo se aterriza de nuevo en la sociedad cómo se empieza de cero qué opinas de la palabra reinserción qué pasos se pueden pedir para que se vaya avanzando y unas cuantas preguntas más en aras de la libertad de información

siempre repito defendiendo la dignidad humana y los valores democráticos

y el reconocimiento y la atención a las víctimas y a la convivencia pacífica como lo viene haciendo eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta egun on lehendakari itzarri es una entidad que gestiona

a comienzos de este año itzarri compró más del tres por ciento del capital de tubacex y se convierte en el cuarto accionista del grupo metalúrgico el presidente de itzarri es el portavoz de su gobierno el señor

tubacex decide invertir fuera de euskadi resulta cuando menos curioso que su propio gobierno tras el anuncio de tubacex de abrir una factoría en cantabria dijera que esa no es la forma de hacer frente a la economía moderna como es la nuestra

la señora tapia decía ese no es nuestro modelo hombre

precisamente en ese modelo en el de buscar las oportunidades fuera

por eso lo pregunto cómo valora la coherencia de su gobierno cuando critica la gestión de una empresa en la que ustedes invierten

es coherente y es deseable que la entidad de previsión social voluntaria de euskadi confíe en empresas vascas es la demostración de que ofrecen ratios de rentabilidad de solvencia y de seguridad iguales o superiores a los de cualquier inversora en el mundo señora quiroga pero

esta es una participación de las funcionarias y de los funcionarios no del gobierno vasco no es dinero público es dinero de las funcionarias y de los funcionarios

le quiero recordar en relación a tubacex que esta empresa tiene dos factorías aquí en araba con mas de mil puestos de trabajo es además una empresa internacionalizada

y su centro de decisión y gobierno en euskadi con inversiones de más de cien millónes de euros es razonable que una empresa realice proyectos de inversión fuera de euskadi aunque lógicamente preferimos y trabajamos para que se realicen aquí en cualquier caso de lo que ha sido la comunicación pública por parte de tubacex en relación a esta inversión este proyecto supone solo

en euskadi cero coma cinco por ciento del empleo

empleos en euskadi no seré yo en todo caso

quien me encuentre satisfecho con cómo se ha comunicado esta decisión y esto es lo que

cuáles son las razones que se han esgrimido para comunicar esta decisión apoyamos a la empresa vasca y apoyamos sus proyectos y su competitividad esta competitividad tiene

no sean el único criterio a la hora de valorar la competitividad lo que deseamos es que el entorno que euskadi pueda ofrecer al mundo de la empresa sea competitivo
y que dé viabilidad a los proyectos productivos este es nuestro objetivo y esto es lo que buscamos también en tubacex eskerrik asko lehendakari jauna

defender sus intereses fuera de euskadi lo cual sin duda afecta al país vasco a la creciente deslocalización de nuestro tejido

de esa entidad que usted dice que ahora no es pública es el señor erkoreka la cuestión es por qué su gobierno critica públicamente la libre decisión de una empresa

y al mismo tiempo sin decirlo públicamente oculta que otra parte que su gobierno participa en esa misma empresa

esa doble moral en la que ustedes siguen atrapados atrapados en una ideología en un modelo de país que sencillamente

euskadi no puede vivir aislada tenemos que ser una sociedad abierta que busque aquí y allí en euskadi fuera de euskadi lo mejor para nuestros intereses lo mejor para los vascos no deben huir de la realidad

y la realidad es que su gobierno critica a empresas que siguen en euskadi gracias a que se ha invertido en otros lugares huir de la realidad es no darse cuenta de que eso es necesario y que lo que debemos buscar en euskadi debemos buscar que sea un lugar atractivo otros vengan aquí que es lo que no está ocurriendo están huyendo de la realidad y huyen porque cuando no admiten que o colaboramos con los demás o nos abrimos a los demás o participamos con naturalidad en españa y con el mundo nos estamos

despierten por favor se acabó la rigidez la rigidez política la rigidez del modelo de trabajo ábranse seamos competitivos y digan la verdad porque hay algo que ha omitido

los criterios de inversión de itzarri lo dicen sus estatutos se orientarán al desarrollo económico y social de la comunidad autónoma de euskadi

no sé si lo que está pidiendo usted es que desinvirtamos o que itzarri desinvierta

le tengo que recordar que hay una junta general de accionistas en la que no se comunica esta decisión

insiste usted en utilizar una decisión empresarial para criticar al gobierno vasco y dice que es

le quiero decir que un elemento de incertidumbre en la competitividad empresarial es por ejemplo el sistema energético señora quiroga

sí están dificultando seriamente la competitividad de las empresas vascas

hace unos meses con motivo de su cincuenta aniversario en este encuentro se habló de innovación porque con ayuda del gobierno vasco

que puede volver a posicionar a la empresa de forma muy competitiva para las próximas décadas

se realicen en euskadi y que la competitividad global nos lo permita

que conforman las quince mayores empresas del estado cita euskadi estas son nuestras fortalezas este es nuestro atractivo estas son las ventajas competitivas que hacen que una amplia representación de empresas norteamericanas hayan

señor lehendakari esta pregunta se la dirijo directamente a usted porque me parece un asunto muy relevante

el miércoles seis de noviembre la radio pública vasca entrevistó y dio voz a un miembro de eta que fue condenado a decenas de años de cárcel

sino que se sigue justificando la violencia terrorista y sus fechorías

entrevista justificar la violencia terrorista

en dicha entrevista se permitió además insultar gratuitamente a las asociaciones de víctimas del terrorismo mayoritarias del país vasco y del conjunto de españa

no es democráticamente aceptable que los medios públicos de comunicación que pagamos con nuestros impuestos todos los ciudadanos vascos incluidas las víctimas del terrorismo dediquen horas y horas a entrevistar a portavoces

o a informar sobre las actividades de las organizaciones filoetarras las asociaciones ilegalizadas las organizaciones afines a la cosa

no es democráticamente aceptable se entrevista incluso en esta ocasión a un etarra no arrepentido y no reinsertado

disparate una desfachatez y una vergüenza mayúscula no es democráticamente aceptable que se pretenda desde los medios públicos de comunicación

la idea de que son tan legítimas las ideas de los que justifican el terrorismo como las de cualquier ciudadano demócrata que por cierto la consejera de educación hace escasos minutos acaba de volver a hacerlo no es tan legítimo no es tan respetable en absoluto puede serlo de un terrorista que las ideas de un ciudadano o las ideas de maite pagaza es absolutamente inaceptable que esto se haya dicho aquí hace escasos minutos por parte de la consejera de educación que se compare las declaraciones de un miembro de eta con las declaraciones de una víctima del terrorismo como si fueran igualmente respetables más teniendo en cuenta que este lo que ha hecho en nuestros medios de comunicación ha sido justificar el terrorismo justificar sus fechorías e insultar a las víctimas del terrorismo es absolutamente inaceptable y una vergüenza mayúscula

censurar de manera contundente en definitiva esta es la forma que tiene e i te be de deslegitimar el terrorismo de defender a la sociedad democrática
y de defender a las víctimas del terrorismo cómo lo ve usted señor lehendakari eskerrik asko maneiro jauna jaurlaritzaren

que no es democráticamente aceptable que los medios públicos de comunicación dediquen horas y horas a entrevistar a portavoces del entramado

las asociaciones ilegalizadas las organizaciones afines a la cosa

gracias presidenta señora consejera efectivamente ningún demócrata puede entender que e i te be entreviste
a un etarra no arrepentido y que va a la radio

no lo entiende absolutamente nadie no lo entiende ningún demócrata ustedes cuenta de esto e i te be entrevistaría a un violador

y denigrar a sus víctimas respóndame por favor esto lo haría e i te be e i te be entrevistaría a un violador le daría cancha

insultara a sus víctimas y el entrevistador preguntara sin más como si fuera un ciudadano normal que fuera ahí a dar una opinión como cualquier otra no se da cuenta usted y usted señor lehendakari que esto es una absoluta vergüenza

señor maneiro por qué no se ha planteado esta pregunta cuando recientemente e i te be

condenado por los gal eitbk

hori dio legeak la función y misión del medio de comunicación de e i te be lo establece la ley cinco barra mil novecientos ochenta y dos de su creación

se ciñe estrictamente objetividad veracidad imparcialidad distinción entre información y opinión igualdad pluralismo político religioso social

defensa y promoción de valores cívicos y de la convivencia etcétera adierazpen eta informazio askatasuna alde batetik eta bortxakeria eta indarkeria guztien erabateko

gracias señora presidenta señor lehendakari egun on señores consejeros señorías para comenzar quería muy brevemente

mostrar toda nuestra solidaridad apoyo y compresión por las últimas informaciones también aparecidas hoy en muchos medios de comunicación con los trabajadores y familias afectadas por la situación por la que atraviesa fagor la mayor empresa

de euskadi mondragón y también la séptima corporación de euskadi

y más allá de mensajes bolivarianos o intervencionistas desde el respeto a los gestores y a sus decisiones manifestarle al señor lehendakari que siempre apoyaremos soluciones sensatas y siempre apoyaremos que la intervención de los poderes públicos debe estar basada en el rigor y la responsabilidad

y generación de empleo seria y también responsable pero tengo que decirle señor lehendakari que al contrario de esto la sensación generalizada

ha sido de que esta situación les ha desbordado y les ha venido grande

no queremos saber solo qué qué es lo que ustedes han hecho que también

de cómo han hecho algunas cosas y el porqué de determinadas manifestaciones cuando se hace pública

la reacción del gobierno vasco lejos de aportar tranquilidad señor lehendakari

algo mínimamente cercano a lo que pudiera definirse como liderazgo ha sido más bien todo lo contrario

más grande que más ha afectado que más ha removido los cimientos de nuestra política y de nuestra industria

ha sido la siguiente el diecisiete de octubre la señora tapia al presentar el concurso de acreedores criticó una decisión tan extrema

el plan de viabilidad por presentar hondas dificultades y afirmó que presenten otro más ajustado y realista el dieciocho de octubre aparece el señor erkoreka y demanda a los responsables que trabajen hasta la extenuación

se supone que hasta entonces habían estado de vacaciones y sin orden también cabe preguntarse hasta qué punto le corresponde a un dirigente político meterse de semejante manera en los problemas de una empresa cuando antes no habían dicho absolutamente nada pero seguimos el diecinueve de octubre vuelve la señora tapia y afirma

que no nos han pillado con el pie cambiado somos conocedores de la situación desde que llegamos al gobierno y entonces habían aceptado lo que la misma consejera

otra entrevista con la señora tapia en la que afirma hemos gastado cincuenta millónes de euros seremos flexibles pero exigentes con el plan de viabilidad es decir que no habían sido exigentes ni diligentes hasta entonces el veinte de octubre aparece usted

y todo esto es información en prensa dice los cincuenta millónes fueron para un plan de viabilidad

aquí empezamos ya a meternos en un jardín no para tapar agujeros es decir dieron dinero para un plan de viabilidad pero piden otro dieron dinero para un mal plan de viabilidad también el veinte de octubre y en esta ocasión aparece el señor

de que fagor no utilizó eficazmente las ayudas recibidas por parte del ejecutivo ya que la inyección económica no se destinó a acometer

que era el destino de los mismos cierro comillas fin de cita no utilizó eficazmente las ayudas recibidas es decir

sino que el dinero fue utilizado fraudulentamente aunque se pide otro plan de viabilidad el veintiuno de octubre vuelve a aparecer usted señor lehendakari

un plan de viabilidad que mantenga el valor añadido que tiene es decir vuelta otra vez

pero lo hace además enredando un poco en este caso acusando al diputado general de gipuzkoa el señor garitano de lavarse las manos en el conflicto

en una situación tan grave como la que estamos viviendo y con la que están padeciendo miles de familias en este tipo de juegos el veintidós de octubre vuelve otra vez la señora tapia y afirma que faltaron decisiones

consejera que había afirmado que no les había pillado con el pie cambiado porque desde el principio de su gobierno

pero por lo visto no les habían pedido entonces decisiones drásticas y rápidas es cuando el problema ha estallado cuando

a exigir decisiones drásticas y rápidas vuelve el veintiocho de octubre el señor ortuzar y dice que está pasando el tiempo y la sociedad y las instituciones necesitan saber hacia donde se quiere ir lo que no especificó

los que no sabían hacia donde querían ir y añade el señor ortuzar

entendiendo que esta es una expresión que busca cierta el gobierno vasco se involucrará a tope lo que suponía que ya estaba pasando

porque habían concedido ayudas porque conocían los planes de viabilidad y porque exigían rigor en palabras de miembros de su gobierno pero el señor ortuzar dice que ahora se van a implicar a tope

día veintiocho que estas cosas no suceden de la noche

lo que no parece señor lehendakari que haya sido así

y el veintiocho de octubre también aparece ya lo siento el señor aburto

y en una entrevista afirma si se hubieran tomado algunas antes algunas decisiones

quizás estaría en otra situación frase tan obvia señor aburto como vacía señor lehendakari

no es serio no ha sido seria su actitud ni la respuesta del gobierno no ha sido seria

no han estado a la altura de las circunstancias y estamos hablando es cierto de una de las empresas

que pertenece como he dicho a la primera corporación empresarial vasca y a la séptima de españa no estamos hablando estamos hablando de una empresa con mil seiscientos treinta trabajadores en euskadi

y se estima además por si esto no fuera poco que su caída

y su reacción la reacción de su gobierno ha sido la que he descrito ha sido la confusión

porque la pregunta señor lehendakari es muy directa y es qué han hecho realmente

de despropósitos en prensa de mensajes confusos aclárenos

desde que llegaron al gobierno y otra pregunta también señor lehendakari quizás más importante cómo controlan ustedes el dinero público que destinan a una empresa

que cumple con los objetivos requeridos cómo es posible que dirigentes del partido que sustenta su gobierno afirmen con rotundidad

no es utilizado adecuadamente qué pasa en este gobierno qué están haciendo ustedes

a decirles dónde tienen que invertir y dónde no tienen que invertir a reñirles a darles dinero sin mirar cómo lo utilizan cuando no funciona echarles en cara que no lo han utilizado bien cuál es su política industrial señor lehendakari

saben ustedes hacia donde van quieren ir a algún sitio van a dedicar la política industrial del gobierno a declaraciones confusas en prensa van a salir los cuatro ortuzar el señor egibar se va a sumar alguien más cuándo van a aplicar algo básico como es

cuándo van a empezar a gobernar cuándo van a aplicar algo tan fundamental en la economía como es confianza en las instituciones

amnésico no sé cuántas cosas le podría decir de su intervención

sí le pediría que fuera más riguroso al traer aquí una intervención vacía de contenido basada en lo que puedan ser utilización de hemeroteca y tire de usted de hemeroteca anterior de lo que yo mismo he dicho en días anteriores a los que usted ha tomado como referencia inicial

en todo caso el propósito del lehendakari y de su gobierno es cuidar el tejido industrial en nuestro país para fomentar el empleo y el valor añadido de nuestra industria el sentimiento actual y voy a empezar por aquí

creo que es la palabra con la que toda la sociedad vasca está afrontando las últimas semanas con la situación de fagor electrodomésticos y de todo el entorno empresarial al que ha afectado conmoción porque esta compañía ha sido y es uno de los referentes de este país en lo que ha producción industrial y posición en el mercado se refiere conmoción

y conmoción por las repercusiones laborales sociales y económicas que supone

pero esta situación no es una novedad señor sémper todas las empresas vascas han tenido que afrontar la crisis económica son muchas las que han acudido a plantear su situación y a demandar un apoyo y el gobierno vasco desde el primer minuto ha tenido que afrontar estas situaciones extremas de empresas y una de las primeras fue precisamente la de fagor electrodomésticos

la de colaborar la de coparticipar en la búsqueda de la viabilidad económica junto a la propia empresa y el conjunto de la corporación señor sémper junto a otras administraciones y junto a entidades financieras el gobierno vasco quiso participar en el proyecto de viabilidad presentado por la empresa

nuestro modelo de actuación es siempre el mismo la actitud del gobierno vasco con las empresas en dificultades es siempre la misma atender sus demandas solicitar un compromiso de viabilidad y ofrecer las herramientas con las que cuenta la administración pública

en este caso nuestro respaldo se basa también en el compromiso de la propia empresa y de la corporación mondragón coparticipamos en buscar una salida con garantías de viabilidad técnica y económica quisimos coparticipar

lo vuelvo a decir lo hicimos y lo volveremos a hacer lo hicimos porque la propia mondragón corporación

y garantizaron la viabilidad se comprometieron aportando financiación propia y se comprometieron con un plan de viabilidad lo importante es que la propia corporación mondragón y fagor electrodomésticos

se veían capaces de garantizar el futuro de la firma y lo hacían con compromiso financiero de la propia corporación y de otras entidades financieras por eso el gobierno vasco se sumó a buscar vías de financiación qué es lo que hemos hecho

y el gobierno vasco recibe el plan de viabilidad por parte de la compañía este plan era ambicioso y muy ajustado en cantidades y tiempos establecía como objetivos

para fabricar la línea blanca en la planta de polonia desinvertir en las líneas de las plantas de francia y consolidar las líneas de mayor valor añadido en las plantas de arrasate

por el plan era de doscientos sesenta y tres millónes de euros como he contestado en la pregunta anterior y el origen de estos fondos era el siguiente

por valor de ochenta millónes esta desinversión se encontraba ya en proceso de ejecución ampliación de capital de los socios de fagor estaba ya

esta decisión prestamos intercooperativos por buena parte de las cooperativas de mondragón por treinta y tres millónes y este prestamo estaba garantizado por mondragón inversiones aportación con recursos propios por parte de las cooperativas

prestamo participado a fagor electrodomésticos por valor de cuarenta millónes

a aprobar por el gobierno vasco en una cuantía de veinticinco millónes

y prestamo de sesenta millónes del instituto de crédito oficial en apoyo a la única empresa del sector de electrodomésticos en el estado español la empresa contaba con un compromiso verbal del ministerio para acceder a este prestamo ante esta solicitud

se comprometió con el plan de viabilidad el prestamo comprometido con el plan de viabilidad se realizó en tres tramos dos corresponden al gobierno vasco

de diez millónes a través de la sociedad de capital riesgos socade y otro prestamo de quince millónes de euros a través de la sociedad ekarpen

de quince millónes de euros se realizó también a través de ekarpen

cinco meses después el mes de mayo de dos mil trece la corporación mondragón se ve en la necesidad de realizar una nueva dotación de setenta millónes de euros

no solo no logra remontar la situación sino que empeora el objetivo es cubrir las necesidades de financiación inmediatas y urgentes de fagor electrodomésticos

la empresa no logra reencauzar la situación y las dificultades crecen

de octubre de este mismo año la empresa presenta a la corporación

a una reestructuración ordenada un nuevo plan de viabilidad sus necesidades de financiación son de ciento setenta millónes de euros

el consejo general de la corporación aprueba realizar una primera aportación de cincuenta millónes

el objetivo es que la empresa pueda hacer frente a las necesidades más inmediatas de caja

y la corporación para tratar de realizar una inyección financiera que permita reestructurar el grupo tanto en tamaño como en funciones de forma ordenada y controlada

cuando el día catorce de octubre una nueva reunión del consejo general de la corporación deniega los cincuenta millónes de euros para fagor electrodomésticos

la corporación toma la decisión de iniciar la solicitud de preconcurso de acreedores en donostia que se presenta dos días después el dieciséis de octubre

la necesidad de analizar un nuevo plan de viabilidad

que permita salvar lo salvable de la empresa ya inmersa en preconcurso de acreedores

de financiación que permitan evitar el escenario no deseado de concurso de liquidación

destinar cincuenta millónes a cerrar las plantas de francia y pagar a los trabajadores se evitaría de esta forma la situación concursal inmediata en francia donde no hay preconcurso

y destinar entre veinte y cuarenta millónes a hacer frente a aportaciones voluntarias de socios

ya en manos del juez por lo que este podría abrir el concurso de forma inmediata desde el dieciséis de octubre entre los días veintiuno y veintidós de octubre

es presentado al gobierno vasco después es presentado al gobierno vasco es presentado también por la empresa y la corporación

y el gobierno vasco ha avalado las reuniones ante todo tipo de instituciones y entidades fuera de la comunidad autónoma

y en ambas reuniones se plantea la necesidad de acudir a la financiación de forma acordada y coordinada entre cuatro actores la propia corporación el gobierno vasco

el gobierno vasco acepta la propuesta y asume el compromiso de desarrollar el trabajo conjunto con el gobierno del estado representado por el ministro de industria señor soria el gobierno vasco mantiene contactos

a fin de analizar la situación y las posibles actuaciones conjuntas a emprender por su parte la corporación asume el trabajo de presentar

este planteamiento internamente en el grupo tras muchos contactos llegamos al veintiocho de octubre
y treinta de octubre que me parece interesante señalar en la intervención posterior eskerrik asko lehendakari jauna denbora amaitu da

gracias señor lehendakari vamos a ver si yo le pido que me instruya si me he dejado declaraciones suyas

de hecho he tenido que recortar muchas porque es que ya ha visto usted que la lista era larga ustedes se han prodigado han generado confusión

riñendo a unos contradiciéndose entre ustedes generando confusión

vamos a intentar trascender de los mensajes políticos pretendidamente buenistas a la realidad

que ustedes manifiestan una y otra vez apoyamos a la empresa vasca

el ejercicio diario de la gestión política de su gobierno no lo confirma porque una empresa vasca

decide invertir en una comunidad autónoma que está al lado pegando a la nuestra

a una empresa vasca es no es nuestro modelo generando apoyo al tejido

reproches quejas enfados manifestaciones contradictorias confusión

usted habla del plan de viabilidad vamos al plan de viabilidad al primero

el primer plan de viabilidad al que usted ha hecho referencia

estamos de acuerdo en eso y entiendo que sobre un papel ustedes deciden dar

ustedes analizan los papeles o siempre se creen lo que pasa en los papeles hacen una proyección empresarial

o se creen algunos y otros no critican a las empresas cuando esos planes de viabilidad que ustedes han aceptado no funcionan

va a ser así esta la política del gobierno a partir de ahora un gobierno responsable utiliza como política de liderazgo ante una crisis como de la que estamos hablando la de a mí no me miren yo no he tenido nada que ver

aunque yo he estado ahí y he participado lo razonable es que dos ex lehendakaris se tiren los trastos a la cabeza lo razonable es

tanto en gipuzkoa como en el conjunto de euskadi salgan a decir este tipo de cosas de las que he enumerado antes

la seriedad aporta también confianza y el liderazgo que se le presume

y a un gobierno está basado también en la confianza que genera a través de sus manifestaciones

podemos regodearnos en el lamento de lo difícil que son los tiempos por los que atravesamos lo importante es cómo reaccionamos los políticos cómo reaccionarán los líderes los que pretenden ser líderes políticos

de verdad se demuestra la talla y ustedes están acostumbrados a gobernar

y cuando el partido nacionalista vasco tiene que gobernar en un momento de crisis compleja

ustedes no gestionan correctamente y se está demostrando que hay conmoción

de una vez por todas y ustedes sean honestos en toda esta crisis qué han aportado confusión

con la relación de declaraciones a las que antes he hecho mención

o confusión han aportado seguridad en la acción de su gobierno en lo que ustedes han hecho o no esa es la pregunta señor lehendakari el señor erkoreka decía hace unos días con respecto a una decisión de la diputación foral de bizkaia que por fin ha aparecido la luz

que yo mismo en esta mañana he tenido aquí en relación a otras preguntas y en relación a esta cuestión en todo el desarrollo de lo que ha sido la explicación a su primera intervención amnésico también en lo que han sido las intervenciones

con relación a lo que ha sido la actuación del gobierno vasco en esta cuestión

de la corporación en reunión celebrada con el lehendakari

de desarrollo económico y de competitividad y es en ese momento el treinta de octubre cuando se da por finalizado el recorrido de la puesta en marcha del plan de viabilidad

en mi primera intervención he realizado un recorrido por lo acontecido en estos últimos meses la actitud del gobierno vasco a partir de este momento

en los siguientes ámbitos buscar el mantenimiento de toda actividad que se a viable de cara al futuro colaborar con otras instituciones en reducir el impacto social

participar en los planes que se puedan acometer para garantizar el futuro de las familias afectadas y apoyar nuevas actividades que generen nuevas oportunidades el gobierno vasco ha mantenido este último mes reuniones de trabajo con el objetivo de ofrecer su colaboración ante la nueva situación creada por la presentación del preconcurso

de que el gobierno actúa en este caso con la misma actitud con la misma intención y ofreciendo los mismos instrumentos a todas las empresas que se encuentran en dificultades la primera reunión tuvo lugar señor sémper el día veintiuno de octubre entre el departamento de empleo y políticas sociales con la corporación

el departamento ofrece la posibilidad de contribuir a través de lanbide a la formación y el empleo de las personas que se queden sin trabajo la segunda reunión

la empresa se compromete a remitir a lanbide la información necesaria para

del cierre de la empresa así como establecer las medidas ajustadas a las necesidades y perfiles de las personas afectadas esta información permitirá a lanbide realizar un planteamiento de trabajo específico incluyendo en el mismo la financiación

el día seis de noviembre se celebra finalmente en lakua la reunión que había sido convocada para el día cuatro

y el conjunto de las instituciones públicas gobierno vasco diputaciones forales y ayuntamientos afectados el gobierno vasco presenta un plan de medidas

se han visto y se están viendo afectadas en el corto plazo se trata de medidas de diversificación y activación

de la red de proveedores y de apoyo a la ejecución de planes de reestructuración y viabilidad en el medio plazo

y análisis de medidas para relanzar actividades y líneas de negocio que cuentan con oportunidades de futuro además lanbide presenta en la reunión las líneas de trabajo

iniciativas que va a desarrollar en los servicios de atención orientación apoyo al emprendimiento o formación para todas y todos los trabajadores que hayan podido verse afectados el día siete de noviembre señor sémper el gobierno vasco mantiene una reunión de trabajo con el consejo social

y los instrumentos con que cuentan los departamentos del gobierno vasco el gobierno vasco muestra su disposición a colaborar con el escenario

y el empleo no me está atendiendo no me extraña que sea amnésico hoy en esta comparecencia quiero hacer referencia expresa a esos cientos de empresas a esos miles de trabajadores y trabajadoras que están trabajando en actividades vinculadas a fagor

y que también van a sufrir esta crisis de forma directa o indirecta hay muchas empresas afectadas y esta es una crisis sistémica señor sémper las repercusiones de esta crisis son muy superiores a las de la propia empresa fagor electrodomésticos y sus cooperativistas y trabajadores

tenemos instrumentos y tenemos programas de actuación a su servicio y el compromiso del gobierno vasco es seguir trabajando para generar más viabilidad económica para nuestro país

gracias señora presidenta lehendakari existe una tendencia natural humana a descargar la intensidad del dolor la crudeza de lo ocurrido

sin embargo hay momentos hay situaciones hitos

donde se espera altura de miras de quien ha sido elegido para representarnos a todos y este

sino de decenas de etarras que no se han arrepentido de nada nos conduce a un sin quererlo al pasado nos sitúa

de lo que ha sido euskadi y asoman

que vuelven sin arrepentimiento numerosos interrogantes por qué de qué sirvió

y sufrimiento aquellos que un día se fueron a empuñar las armas como buenos patriotas vascos regresan hoy a una euskadi que ha crecido y evolucionado en un régimen de libertades ese por el que ellos decían luchar vuelven treinta o cuarenta años después

con una sociedad que ha evolucionado a pesar de ellos que procura ser mejor a pesar del enorme daño que han hecho que nos han hecho y todo esto para qué recuperar la dignidad de la sociedad

no es fácil pero sí imprescindible y cómo lo hacemos pues no dejando pasar oportunidades como esta para dejar bien claro ante quienes vuelven al país vasco que la democracia

desnudos ante su violencia que no había más ideario político en ellos que el de la violencia y un proyecto

y lo que han sido para los vascos o acaso no vamos a sentir como pueblo vergüenza por todo el daño causado

recuerdo es la palabra clave que conecta el pasado con el presente y el pasado con el futuro recordar significa creer en la humanidad esto escribía el premio nobel de la paz elie wiesel recordar para evitar

por los mismos que hoy vuelven al país vasco protagonistas de la mayor vergüenza para el pueblo vasco es sano es necesario es oportuno lehendakari enfrentarse a los problemas fundamentales relacionados con el recuerdo

y la negación otras sociedades se han enfrentado

y porque lo han hecho hoy pueden presentarse al mundo con la dignidad necesaria si las sociedades recuerdan es solo en tanto que sus instituciones le han dado forma porque la memoria de una sociedad

sino del significado colectivo que se da esa memoria y que pasa de una generación a otra y ese es el paso que yo le pido lehendakari que dé a partir de hoy recordemos

de modo que no cuente ni signifique sino como una cifra de su macabra contabilidad guerrera nuestro proyecto aspira a que ese ser humano cuente como tal

no podemos engañarnos no deberíamos olvidar

ideológica del terrorismo y todavía sigue habiéndola no deberíamos olvidar y nos engañaríamos si lo hiciéramos que se ha glorificado a terroristas como soldados heroicos de un ejercito de liberación

de esas mujeres que regresaban viudas a sus lugares de origen

han sido fruto también de la indiferencia de una sociedad que fingía normalidad para no ver la anomalía sangrante de la violencia no puede haber odio no pero tampoco un borrón y cuenta nueva porque no es saludable nuestra sociedad lehendakari

de intentar mirar hacia adelante reponiéndose de los golpes sufridos lehendakari esta sociedad va a transitar sobre un proceso

que hubo más de ochocientos víctimas inocentes ni siquiera ha pasado el tiempo suficiente en euskadi como para reponerse de las heridas

para que esta sociedad recupere su alma su nobleza su esencia es necesario que quien nos representa a todos subraye lo inaceptable e irrepetible huyamos de las mezquindades y acordémonos

es un pulso contra el olvido lo que le pedimos lehendakari que lidere sería un error pensar que la sociedad solo se reconcilia

porque esta sociedad tiene que ser capaz de lograr la concordia pero nunca desde el olvido hay momentos importantes lehendakari y este lo es

pero los ha habido y este momento es una oportunidad para enaltecer los valores que no podemos olvidar los de la democracia

tiempo perdido le lanzo un reto lehendakari el reto de entender que la sociedad debe recuperarse y que su recuperación pasa por este momento y por eso le pido valentía es más

ustedes ahora la oportunidad de ser por fin valientes tan difícil le resultaría hoy admitir que

vamos a decirlo claramente que se escuche claramente

que eta no tendría que haber existido la necesidad de mantener latente la realidad de lo sucedido nos hará más

es imprescindible desde la responsabilidad que usted representa lehendakari

inequívoco para el futuro de nuestra tierra un camino claro marcado delimitado por las normas y principios de la democracia un camino despejado del fanatismo del odio desde esta institución lehendakari desde el parlamento le pido reconocer algo tan básico y crucial para dar un paso más

necesitamos una memoria viva desde el respeto a las víctimas que no se quede solo en el pasado sino que sea relevante para las generaciones venideras

la deslegitimación del terrorismo y el reconocimiento del daño causado

de recuperar el alma de la sociedad vasca como primer paso lehendakari yo le propongo algo muy sencillo y muy importante

nunca y que no ocurrirá nunca más y solo eso es un ejercicio muy sencillo muy fácil no lo hagamos más complejo

nunca todos y cada uno de los vascos tenemos que entender

sino luchando por la memoria con significado político de quienes fueron víctimas de un proyecto político y enfrentándose a este hecho con todas las consecuencias

y recuperar la dignidad de los vascos aquella que nunca debimos perder la que emborronaron los mismos que ahora regresan a nuestra tierra

digámoslo claro no es tan difícil y además lehendakari
lo necesitamos gracias eskerrik asko quiroga

eta nunca debió haber existido de la misma manera que a su compañero

le pido a usted que tire de hemeroteca y de intervenciones mías en esta misma tribuna sobre si no he dicho literalmente que eta nunca debió haber existido señora quiroga valoro

ahora me va a permitir en todo caso que haga referencia a los antecedentes a las declaraciones que usted realizó en la comparecencia pública

y me preocupa constatar la presión a la que está sometido el partido popular en euskadi

lo demuestra la dualidad de las declaraciones de sus propios representantes en función de que apelen a un nuevo tiempo

por este motivo según las coyunturas de cada semana se sienten ustedes obligados a plantear periódicamente

como para satisfacer a los sectores que les están presionando y condicionando puedo llegar a entender señora quiroga

no me pida que les secunde esta táctica que no conduce a nada

un ofrecimiento por nuestra parte para emprender otro método de trabajo desde la base de la discreción y con el objetivo de compartir iniciativas constructivas que nos ayuden a sumar a responder a la oportunidad con la que nos encontramos

mire estoy muy acostumbrado a recibir críticas por supuestas ambigüedades

apelaciones a la altura de miras apelaciones a la valentía sobre algo que hemos sido los primeros en decir los primeros en decir el partido nacionalista vasco y yo en este momento también como lehendakari y antes de ser lehendakari

acostumbrado pero tengo la conciencia muy tranquila y no tengo

no quiero que albergue usted ninguna duda defendemos y vamos a promover siempre una revisión crítica del pasado que explique con claridad la injusticia del daño que ha causado el terrorismo de eta

las violaciones de los derechos humanos que hemos sufrido en este país supuestamente por razón y o justificación política que también ha habido otras violencias justificadas políticamente un daño causado a personas concretas a víctimas y familiares que han sufrido

y como grupo parlamentario y como partido nacionalista vasco hemos mantenido siempre un posicionamiento ético contra el terrorismo siempre

pero con toda la rotundidad nuestro posicionamiento ético ha sido siempre nítido y claro

usted ha hecho referencia desde hace dos años vivimos un nuevo momento en euskadi un nuevo tiempo en euskadi distinto estamos en un momento histórico realmente importante tenemos posibilidad y tenemos ante nosotros la posibilidad

y tenemos que hacerlo y vamos a hacerlo sobre unas bases éticas sobre unas bases éticas y democráticas sólidas y auténticas sabemos que mantenemos diferencias sobre las que tenemos que hablar para buscar acuerdos entre todos y todas pero este no es el método nos debemos a nosotros mismo un modelo de relación

que nos permita aportar acordar y avanzar la ponencia parlamentaria señora quiroga la ponencia parlamentaria o cualquier otro espacio

le invito nuevamente a este trabajo constructivo serio alejado de la búsqueda de

mire señora quiroga si analizo el contenido de su interpelación usted está pidiendo que añadamos a las condenas cumplidas un plus de castigo

ni precedente legal usted está pidiendo en este parlamento que de forma directa o indirecta reprochemos el fallo del tribunal europeo de derechos humanos de estrasburgo sobre la doctrina parot señora quiroga sencillamente

personas que han hecho una reflexión crítica del pasado y que han reconocido el daño causado hablemos de esta cuestión seriamente el gobierno español

que han explicitado el reconocimiento del daño causado que han hecho una reflexión crítica

y que solo están demandando el cumplimiento estricto de la legislación penitenciaria hablemos actuemos y avancemos en este caso respondamos con hechos con hechos a los principios que defendemos apliquemos en la práctica lo que propugnamos en la teoría

y me gustaría que los representantes políticos ofreciéramos a la sociedad un ejemplo me gustaría que la sociedad

los objetivos los principios y los valores que fundamentan nuestra actuación usted hoy propone organizar un reproche social permanente contra los presos y presas que son puestas en libertad

esta propuesta la ha realizado su partido en determinados ayuntamientos y se han quedado solos pretende usted que el lehendakari proponga una iniciativa

cuando ustedes se han quedado solos en las iniciativas que han presentado no es posible

onartutako adierazpen hori irakurtzea zen señora quiroga permítame decirle que me parece un error que usted y su partido no participaran

un acto en el que dábamos lectura al principio básico del suelo ético que su grupo había aprobado previamente

demanda un compromiso mínimo y el primero de todos es fundamentar nuestra actuación

dicho de otra manera pido que antes de enfrentar este tipo de debates es muy importante tener bien definido el marco de principios

nuestra actuación le reitero lo más importante señora nuestra invitación a que participe en la ponencia de paz y convivencia en este parlamento pero también la invitación

estaba preparando esta interpelación y pensaba en las posibles respuestas que iba a tener por su parte esta

no puede ser no puede ser que ante la evidencia del momento que estamos viviendo lehendakari estamos hablando de no uno dos o tres presos de eta que abandonan la cárcel y muchos de ellos además lo tenemos que decir que es verdad que la doctrina parot se les ha aplicado y salen unos meses antes pero se va a producir una realidad y la realidad es que ya cumplen la condena muchos de ellos

cuando sabe que eso no es así y estoy hablando yo lehendakari yo arantza quiroga que antes y después de determinados momentos he dicho claramente que había que cumplir lo que decía

yo le estoy hablando de un momento muy concreto y usted me dice aquí

nunca tenía que haber existido póngalo por escrito

aparece así sabe lo que pasa cuando le estaba escuchando todo su sentido unas palabras que hace poco le escuchamos aquí al portavoz de su partido en el parlamento dirigiéndose a bildu les dijo

esta es la realidad lehendakari pero se engaña

porque no afrontar la historia de verdad que ha ocurrido en el país vasco no va a cerrar las heridas del futuro y lo que es peor no va a contribuir a crear una sociedad democrática plena y libre porque están ustedes

lo que plantea es desmemoriar aquí ha habido violencias por todos lados

destacar más unos de otros yo le estoy planteando algo muy concreto y un pronunciamiento muy concreto yo no le he hablado de cada una de esas personas que ahora salen de la cárcel y se enfrentan ante una realidad

no lo que le estoy planteando va mucho más allá y usted lo sabe

pero eso supone también para ustedes salirse de una dinámica en la que están muy cómodos

ante el espejo de lo que ha sido la sociedad vasca de lo que yo le he descrito si todos y cada uno de nosotros tenemos una historia detrás en la que sabemos que no hemos tenido un comportamiento suficientemente a la altura de las circunstancias se lo digo yo que milito en el partido popular vasco

nada pero que tenemos ahora

de decir las cosas claras eta no existir solo eso pónganlo por escrito vamos a llevarlo vamos a ponerlo en el frontispicio de todas nuestras instituciones

muy seriamente lo dice pero hacer eso se da cuenta que usted a la hora de hablarme de eta

tirar del resto de víctimas lehendakari le hemos hecho un planteamiento

que es necesario para construir que lo han hecho otras sociedades que también han sido

y le pedimos que usted como lehendakari lo lidere se trata de que como sociedad afrontemos lo que hemos vivido lo reconozcamos

eso es lo que le estamos pidiendo lehendakari eskerrik asko quiroga andrea

me abrocho la chaqueta y no para que me imite usted al abrocharme la chaqueta un gesto de cortesía nada más como puede ser cualquier otro en todo caso qué me está usted pidiendo

ya lo he dicho lo he dicho desde el frontispicio como usted apela a mi intervención política desde que me afilié al partido nacionalista vasco

a todo lo que es una trayectoria personal o a una trayectoria colectiva del partido nacionalista vasco le pondré dos hitos desde el bakea behar dugu que el partido nacionalista vasco promovió en todas las instituciones y todos los discursos que desde el bakea behar dugu ha proferido el partido nacionalista vasco hasta el documento

del partido nacionalista vasco para que tenga usted la referencia de lo que es la política del partido nacionalista vasco antes

en relación a los principios éticos a los valores democráticos a las propuestas de solución a un problema político no mezclándolo con lo que es un problema

señora quiroga le reitero lo más importante si de lo que se trata es de que yo diga que eta nunca debió haber existido

y lo más importante nuestra invitación a que participe en la ponencia de paz y convivencia de este parlamento

en ese foro conjuntamente con todas las formaciones políticas cuáles son sus propuestas las iniciativas que considere oportuna no solamente pedir al lehendakari que diga que eta nunca debió de haber existido

cuáles son las iniciativas para aportar caminos de convivencia en esta sociedad vasca que tiene el partido popular del país vasco

la invitación a realizar un trabajo discreto serio y eficaz señora quiroga la invitación a compartir una reflexión y una revisión crítica del pasado ese espíritu va a estar recogido también

lanzando la pelota a la ponencia parlamentaria el espíritu del plan de paz y convivencia del gobierno vasco con tres propuestas de acuerdo

en el que hemos realizado un esfuerzo de integración de todas las propuestas recibidas y un plan que va a aprobar el gobierno vasco el martes veintiséis de noviembre

que plantea una mirada al pasado al presente y al futuro y fíjese pasado ya hemos dicho lo que hemos decidido con respecto a la lectura del acuerdo parlamentario que usted suscribió el pasado catorce de marzo presente

nos comprometemos a que el fin de la violencia de eta no suponga pasar página sin clarificación reconocimiento ni crítica explícita sobre lo sucedido

del gobierno vasco nos comprometemos a que la memoria y el honor de las víctimas

nos comprometemos a no rescribir una historia justificadora de la violencia o las vulneraciones de derechos humanos así como a oponernos a ella y rechazar su uso

sin equiparaciones todas las víctimas también las producidas

reciban el reconocimiento y la reparación que merecen

a que el fin de la violencia no se transforme en revanchismo contra ningún sector sino en integración y vertebración social de la convivencia

la normalización social aborde la cuestión de los presos y la política penitenciaria de un modo acorde a la nueva realidad social señora quiroga y nos comprometemos por fin

y haga posible un proyecto un proceso y un programa de encuentro social un plan que demanda una mirada constructiva y positiva que nos ayude a aprovechar la oportunidad histórica con que nos encontramos

pero me parece importante reseñar una cosa antes de continuar con la reflexión la responsabilidad de este gobierno de este concreto gobierno en todo lo que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los empleados al servicio de la administración general de la comunidad autónoma vasca es nula

porque ninguna de estas medidas que acabo de citar que están en la fuente que están en el origen de esa pérdida de poder adquisitivo ha sido aplicada por este gobierno

dos mil doce los empleados al servicio de la administración general de la comunidad autónoma

una realidad ya consumada para cuando este gobierno tomó posición en diciembre del dos mil doce

se había producido la reducción del cinco por ciento que había impuesto zapatero y su gobierno socialista para los empleados públicos de todas las administraciones públicas

y la supresiones las prohibiciones de las aportaciones a las epsv también se habían consumado por tanto

por tanto la congelación del dos mil trece en la medida en que el presupuesto de dos mil trece ha sido prórroga del dos mil doce es consecuencia de una decisión que alguien adoptó en relación con el presupuesto del dos mil doce

si finalmente la congelación prevista en el proyecto de presupuestos para el dos mil catorce

la pérdida es general la pérdida se ha producido en todas las administraciones públicas porque arranca

y esto se ha defendido de muy diferentes maneras por las distintas administraciones y sus rectores políticos

y no han dado ninguna explicación sobre los motivos por las que las aplican ni si son razones jurídicas ni si son razones económico financieras de la propia institución por ejemplo en ondarroa por ejemplo en donosti por ejemplo en llodio se aplicaron se suprimió la paga extra que impuso rajoy y nadie dio ninguna explicación nadie dio una explicación

josé luis rezabal director general de la función pública de gipuzkoa decía

tal y como proponen los sindicatos mayo del dos mil doce por la misma razón la caída de la recaudación

en otros casos sí se dan razones pero de carácter jurídico las que ha citado usted se cita la normativa básica del estado como es vinculante para todas las administraciones públicas pues bueno nos obliga y por tanto es necesario es obligado en inevitable congelar los sueldos o

por tanto ha habido diferentes maneras de vender estas medidas y también por parte de las administraciones públicas regidas por eh bildu se han optado por unas fórmulas o por otras se han dicho unas cosas y se han dicho las contrarias porque este es un fenómeno general que afecta a todas las administraciones públicas

puesto que arranca de una normativa básica del estado y porque además confluyen motivos de carácter económico financiero como la diputación foral de gipuzkoa que justificaban

y qué se puede hacer ante esto se pueden hacer dos cosas se puede incumplir la normativa básica del estado

algo que hasta donde yo sé no lo hace nadie en ninguna parte

ni en asturias ni en galicia ni en gipuzkoa no lo hace nadie y segunda alternativa intentar esquivar eludir

impedir la aplicación de esa normativa a través de otros procedimientos pero esta es una vía que ya se ha ensayado en este parlamento este mismo parlamento

allá por el año noventa y seis aprueba una ley que pretende eludir esa normativa básica acogiéndose a títulos competenciales propios de la comunidad autónoma

sin embargo el tribunal constitucional en dos sentencias que le recomiendo que lea

dice taxativamente que no hay título competencial ni vasco ni navarro ni foral ni general que autorice a adoptar esta medida en contra de las normas básicas del estado

fórmulas alternativas pero estoy dispuesto a escuchar la suyas no me diga el caso de cataluña por favor porque la referencia que usted ha hecho en el caso de cataluña está muy contestada por los sindicatos de allí

la información relativa a los datos que aporta la comunidad léase lo que dicen los sindicatos en relación con eso y en relación con lo que dice gipuzkoa que va a hacer el año que viene

que eh bildu plantea ahora en relación con los diputados forales de gipuzkoa porque sabe

pero para el año que viene sí porque esto le dará la oportunidad de poder decir yo ya lo quise

vaya nunca acierto con usted señor erkoreka cuando le formulo a usted la pregunta me dice que es a otro al que se la tenía que haber hecho y cuando se la formulo al lehendakari

a ver si para la siguiente a la tercera dicen que es la vencida

enpresek mantenduko dituzten enpresariok edo politikariok nortzuk hoy hemos visto creo que ustedes también lo tendrán en el resumen de prensa que este año ya se han perdido más de cinco mil setecientos diecisiete empleos públicos en la cav por lo tanto

nos preocupa que el poder adquisitivo siga bajando y repito que no solamente por el tema del consumo y demás que cada vez se van

que están tomando los diferentes gobiernos van en detrimento de los derechos laborales

el problema es que para alcanzar acuerdos en este o en otros asuntos pero

el problema es que para alcanzar un acuerdo o para trabajar una aproximación en relación con las medidas

lo que se tiene que producir es una aproximación entre lo que hace este gobierno y lo que eh bildu hace donde gobierna no

porque en ese caso la aproximación es francamente difícil pero es que en ese caso la aproximación es también imposible entre lo que eh bildu dice que hay que hacer donde no gobierna y lo que hace donde gobierna

no aproximación entre nosotros y ustedes sino de entendimiento y coherencia entre ustedes mismos la aproximación por tanto entre lo que este gobierno y lo que eh bildu hace donde gobierna

entre lo que hace el gobierno y lo que eh bildu dice que hay que hacer

quiero empezar diciendo o pidiendo que sean ustedes eficaces al atender las necesidades de fagor

lehendakari cuál ha sido su criterio para conceder desde el gobierno treinta y siete millónes

a principios de año y cuál es su criterio respecto a que fagor haya usado ese dinero para cubrir problemas de caja y no para reflotar la empresa o para inversiones como debía

ni hoy ni siquiera a preguntas de los periodistas en rueda de prensa

que tiene tranquilidad de conciencia de que hemos hecho las cosas como teníamos que hacer

no puede ser que tiene tranquilidad de conciencia sino dar las explicaciones pertinentes

y lo mismo a la consejera de desarrollo económico les hemos tenido que llamar

y sin garantizar que se fuera a cumplir un plan de viabilidad luego la empresa se lo ha gastado en lo que no debía en pagar a proveedores y usted sin controlar nada a pesar de que como dice están en contacto el resultado es fagor electrodomésticos en concurso de acreedores y ekarpen con cuarenta millónes menos

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora presidenta le voy a pedir que

por lo menos si luego se va a volver a preguntar sobre la misma cuestión no haciendo referencia a lo que se ha contestado ya en las preguntas anteriores y tirando otra vez de ruedas de prensa y de hemeroteca no sé para qué tiene sentido las preguntas anteriores

señor reyes el destino de la ayuda del gobierno fue el plan de viabilidad presentado por la empresa y avalado por todos los partícipes del mismo el gobierno vasco participó de este plan y canalizó sus ayudas diez millónes a través de la sociedad de capital riesgo socade y quince a través de la sociedad ekarpen no sé de dónde saca los treinta y siete millónes

y quince los prestamos aprobados por estas dos sociedades estaban dirigidos a cumplir con el plan de viabilidad expuesto y aprobado

mondragón corporación un pool de entidades financieras

y un plan de viabilidad que tiene también su recorrido hacía otras instituciones del estado eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

espero que el lehendakari tenga la dignidad de responder adecuadamente a las preguntas porque respecto al control del dinero y yo le he dicho directamente que no lo ha tenido no me ha respondido y me ha reprochado la pregunta le había dicho el otro día que la autoritas se gana con lo que se hace

bien mire usted dice que ha respondido a un plan de viabilidad no tiene que responder a los informes exigibles habitualmente

normalmente cuando se quiere conceder un crédito ekarpen kutxa

de tres semanas concedió una cantidad importantísima de dinero que si no sabemos exactamente cuál es es porque han mareado la perdiz sin venir aquí a explicar exactamente sí sí

porque si cualquier gobernante está contestado en algo de gran interés social por su actuación si tiene limpia la actuación viene y lo cuenta

doscientos sesenta y tres millónes de un plan de viabilidad

como gobernante porque cuando se concede un aval un dinero una toma de participación para ayudar a una empresa el procedimiento habitual que no sé si conoce supongo que la consejera de desarrollo económico sí ya no no el procedimiento habitual es que cuando hay varias partes el ico mondragón corporación

en la misma notaria para firmar todos a la vez porque nadie se fía que el otro no cumpla y usted ha insinuado hoy aquí que la corporación mondragón le engañó porque no acudió al prestamo que había comprometido y tenía que darle y que por eso y otras razones se estropeó la operación es decir

de no actuar con responsabilidad y diligencia como gobernante eso cuando menos

no le pregunto cuando lo va a recuperar porque es que no lo va a recuperar al tomar participación son fondos propios y ese dinero se ha perdido seguro para la administración pública es un modo de gobernar que muestra tristemente que la leyenda de que el pnv gobierna bien que gestiona bien es falsa lo que pasa que antes en tiempos anteriores había abundancia de dinero y no se veían tanto las posturas pero ahora resulta que si no

el problema que tiene usted es que no le gustan las respuestas que le puedo ofrecer ante eso poco puedo hacer en todo caso

de las empresas para escuchar sus planes para escucharlos para escuchar sus problemas y para ver también sus vías de solución y esta ha sido la actitud del gobierno vasco

afección económica y de grave afección social y el gobierno vasco fue receptivo y solicitamos un plan de viabilidad fue el gobierno el que presentó la solicitud

necesario y sobre esta base y atendiendo al marco legal establecido para las ayudas institucionales es cuando el gobierno vasco decide apoyar el plan de viabilidad recibido y este plan lo he dicho antes

ambicioso y era muy ajustado y establecía medidas dirigidas a proteger las líneas de producción de mayor valor añadido garantizar su continuidad en euskadi así como también

un acuerdo estratégico con una empresa de gran capacidad internacional lo he explicado anteriormente señor reyes

sobre el segundo plan de viabilidad requerido por el propio mondragón corporación y contaba con el respaldo también de las entidades financieras y el destino de la ayuda del gobierno fue el plan de viabilidad presentado por la empresa y avalado por todos los partícipes del mismo

de lo que es esa participación los prestamos aprobados también por la sociedades y cuál fue el destino de la ayuda

no ha podido cumplir su plan por lo que no ha logrado la viabilidad deseada para su actividad

y ha afectado a las entidades financieras y ha afectado también a otras administraciones públicas

este gobierno hizo lo que tenía que hacer contribuir a la viabilidad de la empresa en todo caso

criticar ni a cuestionar actuaciones pasadas y por lo tanto no voy a remontarme a lo que han sido actuaciones pasadas también del gobierno vasco en una línea de avales por veintisiete millónes de euros a fagor electrodomésticos la prioridad del gobierno sigue siendo la misma

crisis y apoyar la viabilidad de las líneas de trabajo y actividad que puedan tener futuro conforme se vaya resolviendo

zurea da hitza sailburu eguerdi on bueno ya hemos hablado en alguna ocasión sobre esta cuestión y

nosotros desde el gobierno socialista abordamos ambas cuestiones con diversas ofertas públicas de empleo que buscaban por un lado cambiar rejuvenecer la administración y también reducir los niveles de interinidad que nos los encontramos en unos niveles altísimos

ronda el ocho por ciento lo cual es una situación bastante anómala tenemos esos retos el envejecimiento y la interinidad y tenemos que construir la administración del siglo veintiuno

dotarlas de nuevas funciones y hay que pensar qué funcionarios tenemos ahora y qué funcionarios vamos a necesitar en el futuro y para eso es muy importante la planificación por lo tanto es por lo que yo le formulo hoy aquí esta pregunta señor consejero si van a realizar ustedes un plan de empleo si van a realizar una planificación de ese plan de empleo y si esta va a ser presentada en la mesa general a los sindicatos

eskerrik asko legebiltzarburu andrea efectivamente señora mendia me plantea usted dos cuestiones que son importantes en este momento en

que aunque están estrechamente relacionados en esencia son distintos

la elevada edad más que el del envejecimiento de la plantilla de la administración general y el de la excesiva temporalidad

el desproporcionado peso que tienen los interinos dentro del conjunto de la plantilla antes de darle una respuesta exacta a lo que me pregunta quisiera hacer una pequeña reflexión general para contextualizar el problema y situarlo en

contexto y en su dimensión concreta porque efectivamente se trata de dos problemas que afectan a un colectivo de personal el de la administración general

del personal del servicio de la administración general y su organismos autónomos es decir afecta a algo más del diez por ciento

pero que es un problema acotado y contextualizado en esas cifras y luego se trata de un problema sobre todo el del envejecimiento de la plantilla que va adquiriendo urgencia es verdad es cierto no lo voy a negar pero que tampoco en este momento

tiene un carácter perentorio angustioso si me permiten la expresión porque es cierto que por ejemplo entre hoy y el año dos mil treinta se jubilarán

pero no es menos verdad que el noventa por ciento de ese ochenta y ocho por ciento no se jubilará antes del año dos mil veinte y que en cualquier caso el año medio de jubilación está situado entorno al dos mil veinticinco por tanto disponemos todavía un cierto margen temporal para empezar a concretamente qué está haciendo este gobierno

todavía en fase muy preliminar estudiando la elaboración de un plan de empleo en el marco de artículo sesenta y nueve del estatuto básico del empleado público

llevando a cabo este grupo de trabajo es actualizar los informes y los documentos que estaban ya en poder de la administración en este sentido actualizarlo incorporando por ejemplo la variable sexo o la variable perfiles lingüísticos que no estaban incorporados y después ha empezado también a entablar a mantener reuniones de trabajo esto es importante con una representación de la administración general del estado a efectos de exponerles cuál es la casuística y la problemática específica que a este respecto vive la administración general

en el ámbito por ejemplo de la reposición de efectivos es muy poco útil para las administraciones autonómicas está bien que nos digan que el

fuerzas armadas en personal del servicio de la acción exterior del estado o en personal del servicio de la seguridad social pero esto la verdad es que para las comunidades autónomas es

ni tampoco tenemos acción exterior del estado en el diseño de la ope no hemos empezado porque las convocatorias públicas como usted bien sabe están estrictamente

de reposición que hoy por hoy es inexorable veremos como se clarifica el panorama de cara al dos mil catorce eskerrik asko erkoreka jauna

mire lo del grupo de trabajo no me parece mal porque siempre es bueno reflexionar pero podemos acabar en la parálisis por el análisis y yo creo que

en las siguientes legislaturas y desde luego debemos de tener informes diferentes porque en el informe que se redactó en la legislatura pasada sí constaba el parámetro

pero en cualquier caso lo que interesa saber es qué tipo de

su gobierno porque lo que está claro es que la relación no la tienen fluida ustedes con los sindicatos no lo digo porque se les hayan levantado de la mesa general sino simplemente por una anécdota que

y ni siquiera tenían conocimiento de ello los sindicatos por lo tanto yo creo que ese es un primer episodio importante y otro señor erkoreka habla usted

nos merecemos una tasa de reposición mayor que nos permita actualizar más y rejuvenecer más la plantilla no no no haga así hágalo reúnase nosotros peleamos con el gobierno de españa una vez establecida la prohibición

y en educación y lo conseguimos sudamos tinta en tres reuniones pero lo conseguimos por lo tanto si hay voluntad se puede conseguir porque la razón puede estar de nuestra parte y por otro lado también me gustaría saber

yo he oído declaraciones diferentes el lehendakari ha dicho en reiteradas ocasiones

en la presentación de la estrategia de reducción del sector público y sin embargo estamos asistiendo a un goteo de despidos continuos en el sector público vasco

y todos por cierto de la mano de la última reforma laboral y al mismo tiempo que estamos sin ope porque usted dice que madrid no nos deja más que el nivel de la tasa de reposición anuncian al mismo tiempo que despiden anuncian nuevas contrataciones y en metaposta despiden a unos para contratar a otros

luego además añadido con la última ceremonia de la confusión que yo se lo trasladé a la directora general de e i te be que es un oferta pública de empleo que aparece en los presupuestos de e i te be de cincuenta plazas

que no existen porque los contratos mercantiles que ahora están en e i te be

y si vamos a las disposiciones adicionales de los presupuestos generales del estado

no en enrede fíjese lo que dice el presupuesto con respecto a esta cuestión

se analizará la posibilidad de convocar ope en este mismo dos mil catorce está bien hacer demagogia haciendo guiños a los sindicatos pero esto es lo que pone en el presupuesto no lo que usted dice

para eliminar la interinidad las que expuso en su primera comparecencia como consejera y lo que fue la realidad